izan diren onenak comentaba que incluso en los cinco últimos años en una crisis muy importante donde nuestro mercado principal es decir el sector del turismo estatal ha estado muy castigado los resultados que ha obtenido el sector

ha sabido mostrar una euskadi como un destino turístico especial atractivo ofrecer servicios de calidad

el pib turístico ha pasado en los últimos años de constituir un cinco coma tres por ciento al cinco coma ocho y ha contribuido con tres

a la economía vasca en estos años pero además el empleo ha crecido en los establecimientos turísticos ha crecido un tres coma veintinueve por ciento en todos y cada uno de los territorios es decir no existe un territorio que haya bajado hemos superado en dos mil catorce el record de visitantes

pero no nos fijamos solamente en el porcentaje de entradas también consideramos como el gasto medio por turista el saldo turístico es decir lo que gastamos los vascos y vascas cuando salimos al exterior y lo que gastan los extranjeros cuando nos visitan

es que desde luego estamos teniendo unos datos estupendos y además nos adaptamos a las necesidades actuales ofreciendo servicios de calidad es bueno que lleguen más turistas a euskadi porque euskadi todavía es un destino joven y que tiene margen de crecimiento pero lo más importante es lo que aportan las personas que trabajan en este sector y las personas que nos visitan a la economía del país

en gastronomía en productos culturales en transporte y en definitiva contribuyen a la riqueza de este país y en este punto quiero destacar un cambio de tendencia en estos últimos

el crecimiento del treinta coma tres por ciento de los visitantes extranjeros en euskadi también crecen los estatales pero crecen desde luego muchísimo más en mayor porcentaje los turistas extranjeros y además le doy especial relevancia porque son los que más contribuyen a la generación de riqueza son los que más gastan aquí en euskadi y contribuyen a que esa diferencia entre lo que gastamos nosotros y gastan ellos vaya reduciéndose

en el momento del relevo del delegado del gobierno español en el país vasco es más

tuvieran que recurrir a una entidad privada para ello me parece un error hoy

la propia entidad ha remitido el caso a las autoridades supervisoras y ese tema está siendo juzgado como lehendakari voy a hacer todo lo posible para salvaguardar la reputación de kutxabank

vital para la economía vasca y ejemplo de compromiso con la obra social kutxabank por lo tanto merece mi respeto todo nuestro respeto prudencia y responsabilidad

matute jauna zurea da hitza señor lehendakari usted decía que el control interno ha funcionado
ha funcionado en diferido como diría una representante del partido popular porque ha transcurrido mucho tiempo hasta que ese control interno ha detectado una irregularidad que parece ser

hoy mismo lo podíamos oír en los medios de comunicación a lo largo de todo este tiempo hemos oído a hablar de una ley no escrita de un pacto o de una razón de estado

la irregularidad acaecida en kutxabank qué razón de estado qué ley no escrita

que tiene que permitirle o que tiene que habilitarle para hacer cosas como las que ha hecho en el entorno de mikel cabieces quiénes participan de esa ley no escrita quiénes acuerdan que esa ley no escrita tenga que tener validez y en cualquier caso qué razón de estado

en lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda evitando así desahucios también por parte de kutxabank parece que esas razones de estado no funcionan y también

frágiles cuartadas que obvian una realidad incuestionable que este gobierno que el gobierno del estado español

sobre la violencia o sobre el terrorismo ya tienen de manera pública y notoria

destinadas a proteger la integridad de las personas que se vean amenazadas e incluso ya sea a través de bolsas de trabajo

de algún futuro más halagüeño y sin embargo se ha tenido que recurrir a un subterfugio

de todos y de todas y también hemos oído que se pone en entredicho a kutxabank y se señala que quienes hacemos la denuncia de lo que haya ocurrido y no somos los únicos también hay diferentes medios de comunicación que así lo hacen ponemos en serio riesgo la estabilidad de kutxabank que casi

quien hace mal empleo quien hace mal uso de los fondos de la misma o quienes quieren

irregular y por eso no entendemos que no se apruebe una comisión de investigación en este parlamento porque si nadie desde el poder político tiene nada que ver

con las leyes no escritas pero por desgracia esta realidad no es una realidad

es que por desgracia en esta sociedad en la vasca ya conocemos lo que son las puertas giratorias y hay inspecciones y hay informes de inspección de trabajo

que determinan que en otras casuísticas por ejemplo ibarzaharra ya han existido dos personas que han cobrado altas remuneraciones sin acudir en un caso ni un solo día a su puesto de trabajo sin remitir si quiera ni un solo informe esa es la realidad usted nos dice que no tenía conocimiento pero a la vez vemos cómo un senador del partido nacionalista vasco en este caso el señor iñaki anasagasti señala

de petición de favores que le son negados o que le son privado a la inmensa mayoría de la ciudadanía pero que parecen al acceso de otros y sin embargo también vemos cómo el nuevo presidente se asciende el sueldo de ochocientos mil euros también sin control

usted me pregunta por cuál es mi opinión sobre las presuntas irregularidades y aprovecha su turno de intervención para mezclar aquí toda una serie de juicios de valor que usted

a lo que hayan dicho otras personas o a lo que supuestamente hayan sido otras actuaciones mire en principio le recuerdo el contexto en el que esto sucede y me parece muy importante teniendo además

porque insisto no he tenido participación en ninguna y no me corresponde valorar lo que responsables propios directos hayan adoptado como decisión

ha sido asesinado y me parece que es importante contextualizar también las circunstancias que se daban en el tiempo en el que sucede este hecho habla usted de puertas giratorias

lo que empiezo a entender como error en lo que es el origen por parte de representaciones políticas que podrían haber tenido en el ámbito de lo público institucional

me puede explicar si hay puertas giratorias en la diputación foral de gipuzkoa bien eusko jaurlaritzak zuhurtziaz arduraz eta errespetuz jardungo du

insisto ha sido detectada y comunicada por la propia entidad está siendo juzgada y yo hoy quiero subrayar que al margen de esta cuestión la auditoria interna y la iniciativa de la propia entidad ha sido el mejor aval de la buena gestión seriedad

qué va a hacer como máximo responsable de este gobierno para corregir la más que deficiente gestión desarrollada por el anterior consejero de empleo vivienda y políticas sociales juan mari aburto

no puedo evitar referirme a las circunstancias que han salpicado el nombramiento de su sustituto

no me corresponde y no lo voy a hacer enjuiciar la labor del señor toña como administrados concursal

pero este hecho le interpela directamente a usted como lehendakari a usted

sin embargo como en tantas otras ocasiones cuando se trata de asuntos comprometidos usted y su gobierno han preferido subcontratar las responsabilidades despejar el balón

y le corresponde a usted lehendakari en primera persona valorar si el sustituto del señor aburto reúne o no las exigencias de ejemplaridad y transparencia que se ha impuesto

sin dilaciones porque no puede haber duda alguna sobre a quién se encarga la gestión de asuntos tan importantes como el empleo la vivienda y las políticas sociales

legebiltzarburu andrea eskerrik asko señor pastor creo que tiene usted motivos para ser un poco más prudente antes de calificar como deficiente la

el año dos mil catorce se ha creado empleo neto por primera vez en euskadi desde el inicio de la crisis en el año dos mil ocho se ha logrado cambiar la tendencia no se ha resuelto el problema pero estamos contribuyendo a atenuarlo hablemos de diálogo social la mesa está en marcha

y ha sido un logro del anterior consejero y es un reto para el nuevo consejero

lanbide afirma que este gobierno ha sido incapaz de enderezar su rumbo admite con ello señor pastor que el rumbo venía torcido de la anterior legislatura

en su pregunta o la conciliación hay una realidad incontestable este gobierno ha priorizado el sistema vasco de protección social

dos de cada tres euros hablemos de vivienda la proposición de ley está siendo debatida para ser acordada y aprobada y lo está siendo también en relación con este gobierno por parte de su grupo con diálogo permanente mire la única instrucción dicho todo esto que yo he dado al consejero

mantengo las razones que me llevaron a proponerle esta responsabilidad la confianza en su preparación capacidad y compromiso

también el código ético y como usted sabe el artículo dieciséis punto seis

hasta que haga pública sus decisiones finales y mi compromiso público y también el del consejero es atender la resolución de la comisión de ética

está aquí como consejero del gobierno vasco nombrado por mí sin más eskerrik asko

ética porque la comisión ética entiendo que ni siquiera va a juzgar el comportamiento del señor toña antes de ser consejero se supone que el comité ético

pero es el lehendakari quien se obligó a sí mismo y a su gobierno en ese código ético que vendió como el no va más de la ejemplaridad y es usted

si a la vista de esta circunstancia y aplicando los principios y compromisos asumidos en dicho código el señor toña o seguir siendo miembro de este gobierno así que no se escude en otras instancias para justificar decisiones que parece ser que tiene ya tomadas y hágalo cuanto antes

los asuntos que le competen empleo vivienda y políticas sociales a cuestiones como la lucha contra el desempleo

especialmente a los jóvenes y a los mayores de cuarenta y cinco años como el diálogo social con los agentes sociales que está simplemente planteado como garantizar una vivienda digna

como ofrecer a las familias medidas de apoyo y ayudas a la conciliación

porque se puso en marcha y había deficiencias que ustedes por cierto de forma bastante sangrante quisieron poner en evidencia y que siguen sin resolver dos años después

y no dar pábulo a campañas de desprestigio como las que agita el señor maroto frecuentemente

no resolvió y que ha dejado en barbecho y precisamente porque el trabajo amplio y urgente es rápido y urgente resolver le emplazo a que aquí y ahora nos diga si considera que en el caso del nombrado consejero de empleo vivienda y política sociales se han cumplidos las exigencias de ejemplaridad y transparencia que establece el código ético

qué quiere que le conteste los miembros de la comisión ética que por cierto son de mayoría gubernamental

del empleo de la vivienda y de las políticas sociales eskerrik asko pastor jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

señor pastor entiendo que usted esté confuso y confundido al tener que venir hoy

la más que eficiente gestión desarrollada por el anterior consejero y que mezcle esto con lo que es la situación del señor ángel toña mire le he dicho antes en mi primera intervención permítame señor pastor

respuesta a su pregunta y digo mantengo las razones

esta responsabilidad la confianza en su preparación capacidad y compromiso no confunda usted a la ciudadanía porque

sabe usted que está compuesta por dos y dos personas y que el secretario no vota no intente confundir por lo tanto que responde a una mayoría o en su mayoría a lo que es la directriz del gobierno vasco señor pastor usted y su grupo han aprobado el plan de empleo y reactivación económica hasta el año dos mil dieciséis han participado en su seguimiento y control y dado por bueno su grado de cumplimiento han aprobado el presupuesto de dos mil catorce y también el de dos mil quince ambos con una clara orientación social

han dado la bienvenida a la mesa de diálogo social ustedes participan de todas estas decisiones demandan que se les reconozca por ello y yo lo hago sin ningún problema ahora bien no es creíble que participe y a la vez hablen de una deficiente gestión

hoy aquí como consejero creo que es prueba suficiente de lo que es mi compromiso eskerrik asko lehendakari jauna

gracias señora presidenta muy buenos días lehendakari el pasado veintidós de enero usted fue

y allí conto su plan su modelo territorial o ese plan que usted

del país vasco y mire nos llama la atención

se niega a debatir aquí usted ha trasladado allí ese modelo territorial ese plan que tiene para el futuro de euskadi como si fuera una prioridad para los vascos en esa de confundir siempre sus intereses con los intereses de los vascos

en el país vasco fuera qué va a pasar en un futuro con nuestra nacionalidad que eso es lo que ustedes están tratando de trasladar por eso yo lo que le quiero trasladar señor lehendakari en esta cámara y lo que le queremos preguntar es por qué se resiste a debatir

sobre sus propuestas de futuro para el país vasco por qué se niega a debatir aquí

legebiltzarburu andrea señora quiroga si no dispone usted de la conferencia que yo ofrecí en madrid no tengo ningún problema en facilitársela para que usted se entere cabalmente de lo que yo intervine o de lo que fue mi intervención sí ya que me la está enseñando le pediría por lo tanto rigor en lo que es sus apreciaciones sobre lo que es el contexto conjunto y contenido de la propia conferencia en todo caso he dicho en madrid lo mismo que he dicho en euskadi lo mismo

electoral inspirado en ados y euskadi nación europea señora quiroga el programa de gobierno y lo que he dicho también

son tres propuestas muy sencillas y fáciles de entender he propuesto un método de trabajo diálogo negociación acuerdo y ratificación

la ponencia de autogobierno en la que todas las tradiciones políticas podríamos consensuar los contenidos básicos de futuro y he propuesto un objetivo compartido alcanzar un acuerdo pacto que nos permita avanzar en el autogobierno y lograr un nuevo estatus político para euskadi

lo que vengo defendiendo en orden al contenido de ados insisto el programa electoral basado e inspirado en euskadi nación europea y el programa de gobierno

y el gobierno vasco vamos a poner todo nuestro empeño y esfuerzo en aprovechar este nuevo tiempo para alcanzar este

acuerdo pacto que es lo que considero fundamental para crecer como país y avanzar en el bienestar futuro de la sociedad vasca

acuerdo pacto acuerdo interno en euskadi pacto en el estado eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna quiroga andrea zurea da hitza

lehendakari nosotros le hemos pedido que ese debate lo podamos tener en esta cámara

se merecen saber qué significan todas esas palabras todos esos conceptos que yo he leído en ese discurso que usted pronunció en ese desayuno

con transparencia con valentía a mí lo que me llama la atención de su discurso es que las prioridades que usted establece en ese discurso nada tienen que ver con las prioridades de los vascos

el futuro económico el bienestar social la seguridad en la estabilidad y mire usted les ha hablado

de un nuevo modelo territorial de la comunión de los pueblos del continente y de un nuevo concierto político usted cree

por la comunión de los pueblos del continente o por llegar a fin de mes por la propuesta suya de estado plurinacional o por tener un trabajo estable fundamentalmente los jóvenes por su plan de reinserción de los presos o por la en la seguridad su nuevo concierto político o el escándalo al que estamos sometidos todos los días por la nefasta gestión con la renta de garantía de ingresos por cómo se están gestionando esas ayudas

se niega a afrontar una realidad que es la del fraude en las ayudas sociales por su propuesta para llevarnos a la autodeterminación o por hacernos comulgar

por mucho que intenten aquí escenificar esas palmaditas esas fotos

que ha recibido una sentencia por no cumplir la ley lehendakari esa es la realidad a la que usted se enfrenta esa es la realidad que preocupa a los vascos lehendakari y más allá de que usted quiera escurrir el bulto más allá de que usted quiera evitar enfrentarse a la realidad lo que yo le pido

todo el autogobierno que tenemos toda la capacidad que tenemos los vascos para afrontar los problemas reales de los vascos el empleo el bienestar

no se preocupe estoy acostumbrado y me mantendré acostumbrado hasta que sean las elecciones no sé si municipales forales y generales a que en las sesiones de pleno de control

mire dice que se ha leído pues creo que se lo tiene que volver a leer sinceramente

reactivación económica generación de empleo como primera prioridad

en ese planteamiento el ofrecimiento que he hecho es fácil de entender y a pesar de que usted crea que es mi prioridad por encima de otras necesidades que significan también una prioridad para este gobierno como son la reactivación económica y la generación de empleo a usted le molesta que podamos hablar incluso de acuerdo

y yo le planteo un acuerdo interno en el seno de la sociedad vasca a través de la representación política en este parlamento y un pacto con el estado

y es esto lo que le molesta a usted señora quiroga acuerdo pacto significa que nos corresponde articular un proyecto de consenso

libremente por la sociedad vasca y solo subrayo que es posible y que está en nuestra mano si queremos claro y solo pido que no renunciemos de ante mano al acuerdo

la realidad ha cambiado y este es el momento de la política de las soluciones políticas y tenemos la posibilidad de acordar y de pactar y esto es precisamente el planteamiento que estamos haciendo

a todas y a todos señores consejeros señor lehendakari la pregunta es sencilla y es muy concreta le pregunto por la directora general de e i te be le pregunto si va a proponer su cese le pregunto si mantiene su confianza en la directora general de e i te be la señora

le tengo que recordar que hace una semana esta cámara se pronunció de manera muy clara el cese de la directora general de e i te be este hecho por lo tanto ya es un hecho ya se ha producido ya es una realidad este parlamento ya se ha pronunciado la sociedad vasca por lo tanto a través de este parlamento ya ha dicho claramente que quiere que se destituya que no siga en su cargo la directora general de e i te be lo cierto es que cada uno de los grupos políticos aquí representados dio

su cese pero ese cese se pidió se pidió su destitución de manera por lo tanto yo le pregunto si va a atender la petición de este parlamento si va a proponer su cese si va a respetar a este parlamento nosotros explicamos como llevamos haciéndolo durante varios meses cuáles son nuestras razones hay una absolutamente fundamental y es que e i te be

y al servicio del gobierno vasco e i te be está al servicio de los postulados nacionalistas y en favor de lo que habitualmente defiende

inaceptable pero ya digo cada grupo político explicó cuáles son las razones estas son las nuestras pero lo importante es que esta cámara ya se ha pronunciado

de dar su opinión y su veredicto y lo que se pidió aquí es que sea destituida

de e i te be por estar al servicio del partido nacionalista vasco por estar al servicio de su gobierno por lo tanto la pregunta es clara si va a respetar a este parlamento
si va a proponer su cese eskerrik asko

señor maneiro no desoigo el pronunciamiento de este parlamento nunca lo hago ahora bien tengo que entender y atender las

pero usted sabe bien que la semana pasada se adoptó una decisión sumando votos

con unas razones y sus contrarias señor maneiro usted lo sabe perfectamente

es posible que diferentes partidos políticos por razones distintas y contrapuestas entre sí critiquen la labor profesional de la actual dirección

radio televisión público tan proclive al partido nacionalista vasco como lo que dice usted ser ahora bien

al gobierno no le corresponde ser responsable garantizar la estabilidad

esa es la responsabilidad del gobierno más allá de lo que puedan ser supuestas líneas informativas en cuanto a la conflictividad laboral la dirección general ha cumplido fielmente la decisión del consejo de administración

mediante una convocatoria pública de empleo aprobada por dos tercios del consejo de administración y este mismo consejo es el que puede revocar el acuerdo y si no lo hace la dirección está obligada a aplicar lo acordado

creo que la dirección de e i te be ha demostrado capacidad de gestión los resultados

ha contado con menos recursos y ha logrado mantener los niveles de calidad y audiencia usted podrá criticar su programación informativa pero deberá reconocer

qué triste señor lehendakari que hayamos tenido que escuchar lo que usted acaba de decir

una e i te be que estuviera más al servicio del partido nacionalista vasco de lo que ya está qué triste pues nosotros no nosotros queremos tener una e i te be plural que informe bien

eso nos gustaría tener pero lo que tenemos es una e i te be al servicio del partido nacionalista vasco y del gobierno vasco esta es la realidad y usted lo que tiene que hacer es atender a este parlamento porque este parlamento ya se ha pronunciado

no importan cuáles sean las razones diferentes que animen a los grupos parlamentarios a pedir su dimisión pueden ser efectivamente razones distintas en algunos de los puntos en otros casos son razones semejantes pero lo importante es que hay una mayoría de este parlamento que ha pedido su destitución

que cada grupo tenga el asunto es que este parlamento ya se ha pronunciado y por lo tanto la directora general de e i te be tiene que dimitir

preciso y necesario para seguir en su cargo esta es la realidad por lo tanto su situación en nuestra opinión es absolutamente insostenible no tiene el apoyo de este parlamento únicamente le apoya el partido

está a su servicio usted tiene que proponer aquí su destitución tiene que cesar o proponer el cese de la directora general de e i te be
esto es lo que nosotros seguimos exigiendo a día de hoy eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea mire señor maneiro qué triste que yo tenga que hacer esa apelación
ante tantas acusaciones de lo que es la tendenciosidad informativa de e i te be proclive al partido nacionalista vasco permítame también desahogarme diciendo que ya me gustaría a mí que sinceramente fuera

pero soy lehendakari y soy consciente de lo que es la responsabilidad que la dirección del ente tiene y que también en su línea informativa aplica desde la mayor objetividad posible

críticas con el gobierno como obviamente han de ser como obviamente han de ser ahora bien insisto en que se critica a la dirección de e i te be por un argumento y su contrario

las de la aplicación de un expediente de regulación de empleo son las mismas razones las de usted que las de eh bildu o que las del partido socialista de euskadi o que las del partido popular son las mismas razones yo creo que como lehendakari tengo que atender lo que son las razones de lo que ha sido una votación entre diferentes por razones contrapuestas

la convocatoria pública de empleo y conocida la sentencia judicial solicitó comparecer ante la comisión parlamentaria de control de e i te be y este mismo parlamento convocó a la comisión el día veintitrés de febrero para recibir

lo que resulta paradójico señor maneiro es aprobar el día cinco de febrero una decisión tan radical sin ni siquiera haber escuchado las explicaciones de la directora general

apelando a lo que es la obligación del lehendakari también la obligación eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua

jarraitzen du carlos urquijo valdivieso jauna

bidaltzen ez diotenean ezjakintasunik ez dago argi eta garbi esaten du legeak las entidades locales tienen el deber de remitir a la administración del estado

sí gracias presidenta buenos días de nuevo señor lehendakari nos gustaría conocer su opinión en relación al escándalo de kutxabank recientemente conocido

el gobierno vasco para conocer lo que ha ocurrido y depurar todas las responsabilidades políticas así como las medidas que estaría dispuesto a implementar para que tales hechos

en fin sus reflexiones sobre estos hechos y cómo es posible que hayan ocurrido y si tiene conocimiento de otros hechos semejantes que hayan podido

en kutxabank o fuera de kutxabank y si piensa que deben corregirse los modos de hacer política

porque creo que es de esto en última instancia de lo que estamos hablando de cómo se han comportado

en los últimos tiempos para beneficiar a determinadas personas en contra del interés general de la ciudadanía creo que es esto de lo que estamos hablando y el asunto más importante qué es lo que han hecho los grandes partidos políticos en los últimos tiempos a qué acuerdos oscuros qué pactos oscuros han firmado para beneficiar a determinadas personas que únicamente tenían que cumplir un requisito para ser beneficiarias de determinadas prebendas tener en regla y en vigor

del correspondiente partido político en fin creo que esto es lo que habría que investigar usted decía en respuesta a una pregunta que no tuvo ninguna participación en el asunto y también ha dicho que hará todo lo posible para salvar la reputación de kutxabank bien qué es exactamente lo que usted piensa hacer para salvar la reputación

no supiera o no conociera estos hechos al fin y al cabo en fin se ha hablado de un pacto entre los grandes partidos políticos vascos y creo que el partido nacionalista vasco es

nosotros no podemos creerle a usted cuando dice que usted no conocía esos hechos o al menos nos extraña mucho nos extraña que el partido nacionalista vasco

no sepa exactamente qué es lo que ha venido ocurriendo en kutxabank por lo tanto por todo esto le pregunto en fin los hechos

un breve resumen de la situación desde luego upyd se ha enterado de todo esto por la prensa seguramente

o algunos de los principales dirigentes de los partidos políticos vascos quizás lo conocían estaban dentro estaban en las cajas de ahorros

pero en todo caso lo que hemos podido conocer es lo siguiente es que

que tras una auditoria interna se había detectado un sustancial incremento de la minuta pagada a un despacho de abogados sin que existiera justificación de la misma el resultado de la auditoria interna fue trasladado a los miembros del consejo de administración

de kutxabank consigue el apoyo necesario para que la documentación fuera remitida al banco de españa para su conocimiento el banco de españa

remitir la misma documentación al banco central el caso llega por lo tanto al banco central europeo los responsables de kutxabank mostraron al supervisor europeo las pruebas que demostrarían los pagos irregulares

al ex delegado del gobierno socialista en euskadi el señor mikel cabieces kutxabank remite a la fiscalía documentación sobre el presunto pago irregular

a un despacho de abogados con el que colaboraba el ex delegado del gobierno ex alcalde

y miembro de la ejecutiva socialista el señor mikel cabieces el señor mario fernández ha defendido por su parte la integridad y honestidad de su gestión

y ha manifestado su sorpresa por el comunicado de la entidad que parece según dice dar por sentado unos hechos sobre los que a su vez pide investigación el señor mikel cabieces dimite como miembro de la ejecutiva socialista

socialista el gobierno vasco inicialmente muestra su sorpresa por la denuncia de kutxabank la secretaria general

al partido socialista de euskadi de la relación de cabieces con kutxabank y de la misma forma que el partido nacionalista vasco define el escándalo como un asunto privado entre el señor mario fernández y el señor mikel cabieces que no afectaría ni al partido socialista de euskadi ni al partido nacionalista vasco el partido popular también trata de desvincularse es cuando suceden estos hechos que

de asuntos privados nunca saben nada nunca tienen conocimiento de los hechos nunca tienen ningún tipo de responsabilidad siempre se habla de los asuntos privados

asegura que en el caso de kutxabank no intervino ningún dirigente del partido socialista de euskadi y añadió que son cuestiones particulares de una relación laboral que debe aclararse en la fiscalía la fiscalía de bizkaia abre diligencias de investigación para comprobar si ha habido irregularidades en kutxabank

y realiza las primeras diligencias el director de recursos humanos de kutxabank el señor mario fernández

declaran ante el fiscal hay quien ha firmado que el partido popular y el partido socialista de euskadi pidieron a mario fernández a finales de dos mil once que

durante tres años por el despacho laboralista que trabaja como asesoría externa de kutxabank que lo incorporaría a su equipo y a cambio aumentaría el importe de la iguala mensual que giraba entonces a bbk y semanas más tarde al ya fusionado kutxabank el despacho del señor rafael alcorta habría aceptado el aumento de su iguala con el banco el señor mario fernández reconoce en un comunicado

al señor cabieces y afirma que en dos mil doce un líder del partido popular le solicitó una salida laboral para el ex delegado del gobierno y cita caso similares donde supuestamente se actuó parecida el señor mario fernández no solo fue el economista encargado por el partido nacionalista vasco para lograr la fusión de las tres cajas vascas sino que pilotó la negociación con los principales partidos políticos vascos para alcanzar un acuerdo en el otoño de dos mil once que facilitó que bbk kutxa y caja vital cedieran a kutxabank su actividad bancaria hemos conocido también conocimos en su momento el comunicado

habla de un pacto entre los principales partidos políticos vascos para facilitar una salida laboral a un militante socialista evidentemente el partido nacionalista vasco es uno de esos grandes partidos políticos

lo considera así la fiscalía envía el caso al juzgado y pide imputar al señor fernández señor cabieces y señor alcorta la fiscal ve delito en la operación diseñada por mario fernández para pagar a cabieces se habla de que podríamos estar hablando de tres delitos

apropiación indebida y falsificación de documento mercantil para nosotros esto es un escándalo y evidencia la forma que han tenido de actuar los grandes partidos políticos vascos durante las últimas décadas

no me venga usted a decir que usted no sabía nada que a usted no se le informó que este es un asunto privado qué ocurre aquí que

nadie sabe nunca nada nadie es responsable de nada qué es lo que ha ocurrido aquí

reflexiones qué piensa hacer puesto que ya digo que hace unos minutos ha hablado de que usted está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para devolver la reputación a kutxabank cómo ve el asunto qué piensa hacer gracias

en lo que a mi respecta y en mi caso convierta sus extrañezas en certezas por favor y me gustaría empezar con una constatación kutxabank es la entidad más solvente del sistema financiero español

que las instituciones europeas han destinado para el rescate de los banco y entidades financieras españoles kutxabank es la entidad de todo el estado que en proporción revierte a través de su obra social en iniciativas y actuaciones dirigidas al conjunto de la sociedad además hablamos de una entidad vasca enraizada en euskadi

una entidad que invierte y genera riqueza y empleo en nuestra comunidad y es por fin

que está adoptando la fórmula jurídica que le permita seguir creciendo como una entidad vasca que toma sus decisiones en euskadi usted habla de medidas a adoptar yo quiero poner en valor todas las medidas que se han adoptado durante años y años medidas que han permitido que estas entidades financieras vascas las cajas de ahorros vascas

vaya por lo tanto a todos los ex presidentes y directivos que han hecho esto posible mi reconocimiento quiero remarcar también algo incuestionable

y también kutxabank han contado con una dirección profesional y competente equipos profesionales que han desarrollado con éxito

la labor y los resultados de un equipo profesional que en poco más de un lustro ha procedido a fusionar las tres cajas vascas convirtiéndolas a continuación

a crear y poner en marcha la nueva entidad kutxabank convirtiéndola en la primera entidad del estado en solvencia usted habla de medidas a adoptar y yo quiero poner en valor todas las medidas que este equipo profesional ha adoptado durante estos últimos años

vaya por lo tanto también mi reconocimiento a mario fernández

y en estos momentos la entidad kutxabank cuenta también con una dirección profesional recientemente elegida y que ha actuado siguiendo las reglas más estrictas de control bancario

me piden mi opinión y ya la he expresado

relativa a esta cuestión reitero por mucho que usted pretenda hacer alguna alusión al partido nacionalista vasco con una interpretación forzada de lo que es la mención a los grandes partidos políticos que no creo que es así

en todo caso le reitero convierta su extrañeza ante lo que yo he dicho anteriormente en certeza la secuencia de los hechos es conocido

a día de hoy nadie ha desmentido este relato de los hechos por lo tanto al menos hasta este momento podemos pensar

a todos los medios de comunicación recogen la realidad de lo sucedido yendo a lo que es la pregunta

usted conoce perfectamente nuestro marco de competencias de control y supervisión usted sabe a quién corresponden las competencias en relación al control y supervisión de kutxabank

al banco de españa y al banco central europeo en el mismo momento en el que detectó las presuntas irregularidades que usted cita usted sabe por fin

de la fiscalía usted conoce todas estas medidas y sabe a quién corresponde cada una de ellas señor maneiro y usted sabe más

que el pasado mes de enero el gobierno vasco sometió a información y audiencia pública el anteproyecto de ley que regula las cajas de ahorros y las fundaciones bancarias

no incluye como usted sabe a las entidades bancarias cuya regulación y supervisión corresponde al estado y al banco de españa usted sabe más sabe que kutxabank ha actuado en todo momento con plena autonomía y ha adoptado las decisiones que ha considerado más adecuadas para su entidad

y le garantizo que como gobierno vasco vamos a mantener una medida

nuestra actitud de respeto prudencia y responsabilidad

que debe adoptar una resolución y por otra parte vamos a actuar con prudencia porque el gobierno vasco está comprometido insisto con salvar y salvaguardar la imagen pública y el bien ganado prestigio

finalmente hacemos un llamamiento a la responsabilidad pública para que este episodio que está siendo juzgado a instancias de la propia kutxabank

con el esfuerzo de tantas y tantas personas profesionales sobre la base de la confianza de sus clientes durante una

como lehendakari y en representación de todo el gobierno vasco hemos manifestado y mantenido siempre el máximo respeto a las decisiones soberanas de las cajas vascas y de kutxabank a ellas

las decisiones que mejor entiendan se ajustan a su actividad su futuro su evolución y su posicionamiento en todas

y además siempre hemos adoptado el papel activo de supervisión y control a las cajas que la legislación de que nos hemos dotado en este país nos ha permitido así lo hemos hecho desde posiciones constructivas y con la mirada puesta en preservar

las cajas de ahorros y que la ley establecía como necesaria esta es nuestra responsabilidad señor maneiro y sobre esa responsabilidad actuaremos

valora la gestión llevada a cabo en kutxabank sin embargo yo le puedo recordar por ejemplo que kutxabank es la entidad bancaria que más desahucios ha impulsado en euskadi esto le parece también una buena gestión

se ha acaba de incrementar el sueldo un setenta y tres por ciento

anuales esto también le parece a usted una buena gestión y donde además se ha producido este caso concreto del que le hablo

es posible que se hayan podido producir más pero en todo caso este caso se ha producido y evidentemente todo parece indicar

como consecuencia de un pacto amplio entre los principales partidos políticos vascos y por cierto ustedes estaban dentro

estaban dentro primero de las cajas de ahorros y después de las fundaciones bancarias no solo estaban dentro sino que se peleaban por estar dentro

qué querían sacar a cambio ya sabemos lo que ha ocurrido en otras cajas de ahorros españolas por qué los partidos políticos han venido peleando por estar dentro de las cajas de ahorros y dentro de las fundaciones bancarias parece evidente que querían estar dentro para utilizarlas y ponerlas

yo también sé algunas cosas señor lehendakari yo sé que estamos ante un asunto que es sobre todo un síntoma que evidencia una forma concreta de hacer política en euskadi por parte de los partidos políticos tradicionales son

señor lehendakari son las prácticas viejas de los partidos políticos es la vieja forma de hacer política es el amiguismo y el enchufismo

este caso pero que también se ha producido en otros casos relativos por ejemplo a lo que ha ocurrido en diferentes empresas públicas donde unos partidos y otros

un asunto relacionado con las puertas giratorias de toda la vida con el amiguismo y con el enchufismo por qué los partidos políticos

que no es suya en este caso kutxabank para solventar sus problemas qué es eso de leyes no escritas que se saltan la legalidad vigente que debe sin embargo respetar el común de los ciudadanos no estamos ante una decisión justa como alguno ha pretendido vender sino ante un acto y discriminatorio carente de cobertura jurídica

este caso muestra la forma en que han actuado los partidos políticos viejos durante años en euskadi para repartirse cargos y puestos nuestra opinión y yo le pregunto hay más casos conoce usted más casos cuántos casos más habría en kutxabank

qué otros pactos oscuros han firmado ustedes de espaldas a la ciudadanía para beneficiar a los suyos qué pactos hay

están a día de hoy en vigor para que determinados representantes de los principales partidos políticos vascos estén situados en determinados lugares

pero no sabía nada el partido nacionalista vasco no sabía nada en este caso ese partido que lo sabe todo

en este caso no no tenía información del asunto alguien puede creerse esto en fin ya digo son por lo tanto las puertas giratorias de toda la vida y además yo le preguntaba qué medidas va a implementar usted para recuperar en fin la buena gestión la honorabilidad de kutxabank usted lo ha dicho antes

y ha dicho que no es asunto suyo para terminar hay quien propone en este parlamento la creación de una comisión de investigación que investigue lo ocurrido en este caso yo creo que lo que habría que poner en marcha es una comisión de investigación que analice

la forma de actuar de los viejos partidos políticos en euskadi durante los últimos años esa es la investigación pendiente esa es la comisión de investigación pendiente

ustedes tienen firmados que la inmensa mayoría de la ciudadanía desconoce eskerrik asko maneiro jauna lehendakari jauna zurea da hitza

señor maneiro proponga usted la constitución de esa comisión de investigación confórmela usted solo y juzgue usted solo

mire señor maneiro usted ha hablado de leyes no escritas como si esa mención a las leyes no escritas la hubiéramos hecho algunos de los representantes políticos hoy presentes en la cámara

usted confunde también lo que es la labor de los órganos de control y de dirección en las cajas de ahorro y también en la entidad financiera aludiendo a lo que es el interés de los partidos políticos señor maneiro sabe usted perfectamente cajas de ahorro entidades fundadoras trabajadores

hay presentación de candidaturas tanto de formaciones políticas como sindicatos como también otros agentes sociales señor maneiro son por lo tanto los impositores los que eligen sus órganos de representación

a los órganos de representación elegidos por los propios impositores de las cajas de ahorro mire va a encontrar en mí a un lehendakari que quiere que la situación planteada y juzgada se esclarezca a la mayor brevedad soy el primer interesado

kutxabank y a sus órganos gestores adoptar las medidas necesarias a ella ante la cual el gobierno vasco no tiene

a ella señor maneiro y reconozca usted esta realidad que sea la propia kutxabank la que adopte las medidas necesarias para que estas situaciones en su caso

de kutxabank no ha ofrecido lugar a dudas desde el primer momento ha sido la propia entidad la que ha puesto en marcha

nacionalista vasco ha sido la propia entidad la que ha puesto en marcha una auditoría interna y ha sido la propia kutxabank

creo en el proyecto de kutxabank en el proyecto de un banco vasco profesional sólido y eficaz que invierte en euskadi en sus familias y en sus empresas

a través de la obra social y estas son las medidas en las que creo estoy convencido de que la entidad kutxabank puede salir fortalecida

y yo le propongo medidas para que esto pueda ser así empezando por hacer un llamamiento a la responsabilidad señor maneiro ser responsable es sinónimo

que se tomen las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir y lo hago ser responsable es no utilizar kutxabank como arma política arrojadiza señor maneiro

que este desgraciado episodio pudiera ocasionar y pido la máxima responsabilidad para no poner en riesgo la confianza en la solvencia seriedad y profesionalidad de kutxabank ser responsable señor maneiro

con seriedad también en el ámbito parlamentario en relación a esta cuestión atender a las resoluciones judiciales que están abiertas y no contribuir

de la entidad insisto más solvente del estado y una de las más solventes de europa eskerrik asko

kutxabanki buruz damborenea jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta señor lehendakari intentaré ser muy responsable

la bbk tenía los problemas de que tenía muchas acciones de empresas y sociedades

la vital era demasiado pequeña no podía financiar a empresas alavesas

porque el factor riesgo con una sola empresa le impedía

y la kutxa guipuzcoana con perdón tenía unos líos fantásticos porque se había dedicado a hacer negocios con el ladrillo en toda la costa del mediterráneo español

a nosotros a ustedes y a otros nos pareció que había que tomar una decisión para el futuro de esas cajas

en cómo se mejoraba la competitividad de esas tres cajas de ese banco cómo se crecía y evidentemente no era un modelo el planteado digo modelo euskaltel es decir ya tenemos nuestra compañía de teléfonos operamos aquí somos fantásticos competimos con el mundo mundial aquí

que eso no funcione como ocurrió era para que esa entidad financiera

en el resto de españa y obtuviera beneficios porque las tres cajas tenían ya en aquel momento más del cincuenta por ciento de la cuota de mercado era casi imposible que pudieran incrementarla solo podían ir para abajo

y en eso entramos nosotros tres años después o cuatro

con qué nos encontramos con un banco muy solvente con un banco

pocos beneficios y de hecho el nuevo presidente dijo que venía a ganar dinero

que el banco además de él pero bueno venía a ganar dinero porque era lo que evidentemente tiene que hacer un banco

y no se producen beneficios no hay obra social que es de lo que viven los accionistas que son las tres antiguas cajas de ahorros hoy fundaciones pero qué tenemos hoy

con la excepción de cajasur que ya estaba en la bbk de antes con un cambio de presidente sin explicación de ningún tipo

y qué tenemos hoy además hoy no tres años hoy qué tenemos

que está en el juzgado la contratación del nuevo con el lío de los sueldos que también lo tenemos y hoy también nos desayunamos con que es el propio banco quien está investigando más irregularidades hace un momento el señor lehendakari nos decía hombre que el daño reputacional al banco había que intentar minimizarlo y es evidente que yo sé y todos sabemos que un banco se basa en la confianza

del activo de un banco de otras entidades es posible que otros pero de un banco es la confianza yo no sé si el señor lehendakari piensa que el culebrón que el propio banco está haciendo beneficia

pero bueno es una de las cosas que le pregunto lo que sí quiero decirle es algo porque usted decía antes que aquí nadie ha hablado de las normas no escritas sí

en su defensa alegue lo que quiera pero lo que no puedo entender es que el señor lehendakari en la primera de las preguntas de las cinco que había a la mañana

por no decir quince o veinte días hablando de esas normas no escritas

y que por lo visto sirven para cumplir las normas escritas

y además con un agravante porque al parece se está intentando vender y hoy

de que el fin loable de las medidas justifica los medios y ese fin loable algunos

en el juzgado que estime pertinentes pero lo que no puedo entender señor lehendakari es que usted nos alegue la lucha contra el terrorismo como fin loable para incumplir las normas escritas

no lo hemos admitido nunca y menos que se nos diga que el fin loable es que alguien muy significativo en la lucha contra el terrorismo hay que

que no han recibido nunca un duro entonces me gustaría que si alguien conoce esas normas no escritas o escritas me las diga porque les pasaría la relación

que ha sido muy perjudicada en la lucha contra el terrorismo que ha dado mucho la cara en este país y no ha recibido nada de nadie

pero le repito que esto de que el fin justifica los medios fin muy loable

los medios justifica incumplir las normas lo vemos también con el nombramiento del nuevo consejero como ha beneficiado a los trabajadores no importa que se defraude a la seguridad social o se incumplan todas las normas entonces

cómo el fin si es loable justifica los medios si el beneficiado tiene una justificación más o menos loable eso no importa que se incumplan las normas las escritas quiero decir

yo ya sé que el banco es una entidad privada ya lo sé

pero también sé y usted sabe y todos sabemos que tiene accionistas y usted sabe y todos sabemos quiénes son los accionistas y usted sabe que la bbk tiene el cincuenta y siete por ciento del capital del banco y que es el máximo accionista y usted sabe y yo sé que si los accionistas no controlan

usted como gobierno sí tiene ciertas posibilidades ya sé que de controlar el banco no pero usted mismo ha citado en la anterior interpelación que existe un anteproyecto de ley de cajas de ahorro y fundaciones bancarias que evidentemente le da pie

para establecer medidas para que el accionista en este caso las fundaciones

las antiguas cajas puedan tomar medidas al margen de las propias del propio banco o al margen de los reguladores ya sea el banco de españa o el banco central de europa porque esa

y ese es el único control público que queda de kutxabank los accionistas y ahí sí tiene este gobierno competencia en regular los accionistas

y se cumplan las normas escritas en todo caso y para todo el mundo y eso es lo que nosotros le hemos planteado en esta interpelación al señor lehendakari

visto lo que está pasando este gobierno se está planteando en ese anteproyecto adoptar medidas que permitan a los accionistas en este caso a las fundaciones que sí corresponde a este gobierno y tiene la competencia para regularlos

controles de la gestión del propio banco y no depender de la

que haya dicho que intenta

o que intentará ser responsable yo también y empiezo por preguntarme cuál ha sido el sentido de su intervención atendiendo a lo que es la formulación de la interpelación

justificación de la interpelación planteada por usted es

es evidente que la opinión pública por supuesto negativa pone en cuestión la forma de actuar de kutxabank por sus decisiones políticas

deben cumplir la normativa europea en cuanto a porcentajes de acciones que permitan la despolitización de las antiguas cajas de ahorro

interesa conocer al grupo popular vasco si es intención de su gobierno plantear en la nueva ley de cajas

medidas tendentes a que la transparencia hiere también a las antiguas cajas de ahorro y a sus sucesores es decir bancos y fundaciones

he hecho referencia en la intervención anterior a quién ha hablado de las leyes no escritas yo no he hecho ninguna mención a normas no escritas señor damborenea

en respuesta al grupo parlamentario eh bildu no entiendo que responsables políticos con capacidad para buscar una solución en el ámbito político

tuvieran que recurrir a una entidad privada para ello me parece un error señor damborenea si alguien ha actuado en base a normas no escritas en este caso además no es ni el partidos nacionalista vasco ni el gobierno vasco

no voy a seguir señor damborenea en ese ejercicio de responsabilidad al que me comprometo

a lo que es su interpelación quiero responderle diciéndole que como es público y notorio el gobierno vasco yo inicio el mes pasado

que regula las cajas de ahorros y las fundaciones bancarias a través de su aprobación previa y su comunicación pública y que como es público y notorio también

hoy en fase de alegaciones de las personas interesadas y en información pública general se dejó bien claro el ámbito de regulación que corresponde al gobierno vasco y quiero dejarlo claro hoy también aquí así se indicó que este ámbito

y a las fundaciones bancarias y no a las entidades bancarias cuyo ámbito de regulación y supervisión corresponde al banco de españa

y solo por delimitar el ámbito competencial y el ámbito de pertinencia de la interpelación y entendida esta como limitada a cajas de ahorros y fundaciones bancarias la normativa vigente ya contempla

el ejercicio de las funciones de protectorado y control público de las cajas de ahorros ya contempla el de garantizar el cumplimiento de los principios de democratización de publicidad de profesionalización de independencia así como transparencia en la elección composición y funcionamiento

en este sentido señor damborenea el ordenamiento jurídico ha sido

de manera paulatina mayores requisitos de transparencia en la gestión y funcionamiento para las cajas de ahorros y así mismo también para las fundaciones bancarias por ello lo que le puedo decir es que el gobierno vasco en su

trasladar los principios ya mencionados aplicables a las cajas de ahorros también a las fundaciones bancarias dentro siempre de las competencias que le asisten

corresponde al regulador y supervisor estatal hacer lo propio con las entidades bancarias en general y en este caso con kutxabank en particular

como el supervisor estatal citados son órganos gestionados además por lo que pueda ser el poder o la influencia del partido popular en el ámbito del estado o nombrados a su instancia para terminar

ha de ser un producto del legislativo vasco de este parlamento

como usted interpelante tiene ante sí la posibilidad de mejorar cualquier aspecto del anteproyecto citado presentado por el gobierno vasco eskerrik asko

y está escrito y usted lo ha leído

a usted no le parece raro que cuando la

a kutxabank sea que se quiere privatizar y cuando resulta que se dicen es que se quiere privatizar resulta que es que

instrumento público que controle kutxabank aquí algo falla o algo nos falla a todos

porque si existe el riesgo de privatización y resulta que ya es más privado

por poner un ejemplo no sé cuáles son los planteamientos

pero bueno es evidente cuál es nuestra interpelación nuestra interpelación es si este gobierno a la vista que tiene

para regular en esa ley las fundaciones bancarias y hay una de ellas que tiene el cincuenta y siete por ciento del capital del banco

este gobierno tiene intención de que pueda existir cierto control público y digo cierto porque es que sino

y eso que a ustedes les ponía tan nervioso que les acusaban estos señores de la privatización

las diputaciones no tienen nada que decir los ayuntamientos no tienen nada que decir nada que decir a nadie y esto es lo que causa extrañeza y a nosotros nos causa mucho porque es evidente

el accionista manda en un banco y cuando hay uno que tiene el cincuenta y siete por ciento

por eso se hace por eso se hace por lo tanto esto de que las instituciones públicas no controlan nada pero al margen por lo visto

habrá que regularlo en una ley y evidentemente ustedes sí tienen competencias

cuando venga el proyecto de ley si es que llega algún día porque puede que sí o puede que no ustedes están en fase de anteproyecto

no son las enmiendas que yo voy a hacer cuando yo lo tenga y cuando yo vea lo que ustedes presentan veré si hago enmiendas o no hago enmiendas o mi grupo hace enmiendas o no hace enmiendas pero la interpelación es muy clara si usted que es el lehendakari de este gobierno que tiene competencias para traer aquí el proyecto de ley de cajas y lo están estudiando en el anteproyecto piensa adoptar alguna medida que pueda dar algún control a ese protectorado que el gobierno vasco tiene sobre las fundaciones porque es el gobierno vasco el que las tiene

que de alguna forma permita que esos supuesto fondos públicos porque

nada podemos hacer desde ninguna institución a efectos de controlar nada si tiene usted intención y su gobierno tiene intención

adoptar alguna medida para que el control de las fundaciones que sí es su competencia pueda ser efectivo

cien por ciento y de esos accionistas el responsable y el que regula y legisla es esta cámara y este gobierno y tienen el cien por ciento del banco y que son los que mandan en el banco que ya sabemos que el banco es privado pero tienen accionistas

cien por ciento y no me parece que sea muy responsable que el lehendakari de este gobierno

que se escaquee de la responsabilidad del gobierno en este tema porque como es un banco privado

pero su responsabilidad está en el accionista en el que manda en el banco

si se crece si no se crece si se hace esto o se si hace lo otro si se contrata con unos o se contrata con otros

interpelación es muy clara y muy sencilla es la que le hemos puesto por escrito y la que yo le he dicho aquí

empiezo por decirle que en su intervención usted vuelve a insinuar que se han producido decisiones políticas en kutxabank y he dicho una y mil veces en este foro y ahora repito que el gobierno no va a entrar a calificar y mucho menos valorar las decisiones que libremente corresponde adoptar a una entidad bancaria privada que está supervisada

por las autoridades financieras del estado en lo que hace a la despolitización de las antiguas cajas de ahorros hoy fundaciones bancarias y al respecto

también hemos dicho en muchas ocasiones que siempre ha correspondido al estado dictar la normativa de transposición de la normativa europea oportuna

que este gobierno ha respetado este gobierno por sus competencias estatutarias ha respetado la normativa básica estatal

de tal modo que si algún resquicio de politización pudiera haber

a las autoridades europeas y españolas acepto que pueda plantearse un nuevo esfuerzo al gobierno vasco en esta materia ahora bien solo le pido señor damborenea coherencia porque permítame decirle primero que no entiendo que esta exigencia provenga de un representante del partido popular por qué porque usted está exigiendo aquí aquello que usted y su partido han decidido no plantear en la normativa básica

y si lo querían aquí o si lo quieren aquí solo lo tenían que haber

y si no lo quisieron allí no se entiende que lo proponga aquí pero segundo

porque en la alusión al anteproyecto de ley de cajas de ahorro y de fundaciones bancarias se nos ha acusado también

entidades afectadas de intervencionismo del gobierno vasco pero no solamente por una parte de las instituciones o entidades afectadas sino también por un alto representante político institucional de su propio partido como es el diputado general de araba que ha calificado

señor damborenea por lo tanto pide usted transparencia pero su propuesta me parece que no tiene credibilidad porque carece

y del mínimo de coherencia que usted demanda a los demás eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera

presidenta le pregunto a usted señor lehendakari por la presencia en etb como tertuliano de mikel zubimendi ex miembro de la banda terrorista eta

ni ha pedido perdón a la sociedad o a las víctimas del terrorismo y podemos recordar además que en una de sus apariciones en televisión mostró su estima por el terrorista santi potros le pregunto qué le parece a usted esta decisión

como tertuliano a una persona con esta trayectoria tan vergonzosa estamos hablando de una persona que fue dirigente de jarrai

en este parlamento y donde protagonizó diversos enfrentamientos con la presidencia

llegando a arrojar cal en el escaño del consejero ramón posteriormente abandonó españa huyó a francia para integrarse en eta

de la banda terrorista fue condenado a ocho años de cárcel por los delitos de asociación de malhechores con fines terroristas tenencia ilícita de armas y documentación falsa

eminente de responsabilidad y resulta que a una persona con esta trayectoria se le invita como tertuliano en la televisión pública vasca una vergüenza absoluta por eso le preguntamos a usted si comparte la decisión de dar voz a un personaje con esta trayectoria a nosotros desde luego nos parece una vergüenza y una razón más para pedir la dimisión

egun on señor maneiro en primer lugar quisiera aclarar que la elección de contertulios en los programas de e i te be la realizan responsables de los mismos

en representación de las diversas sensibilidades ideológicas y que conocían con anterioridad la participación de mikel zubimendi en el programa insisto ninguno de ellos

la productora volvió a contactar con él para tomar parte en el segundo debate sobre la corrupción y la salida de la cárcel de luis bárcenas dicho debate tuvo lugar el veintidós de enero y es el que ha originado la polémica al respecto que las opiniones de los contertulios solo representan a sus autores las opiniones vertidas en ese programa por mikel zubimendi le representan únicamente a él

opiniones que por cierto reflejan una escasa sensibilidad por el dolor de las víctimas y que desde luego se sitúan en oposición frontal a la línea editorial de e i te be

el reconocimiento y atención a las víctimas y la convivencia pacífica

señor lehendakari no se atreve a responder usted a esta pregunta es un asunto creo yo lo suficientemente relevante como para que usted dé su opinión en relación a la presencia

en e i te be usted tenía que decir aquí que no está en absoluto de acuerdo con ese planteamiento porque efectivamente se le llamó una vez señora consejera

y luego se le volvió a llamar y usted dice que no ocurrió nada sí ocurrió ocurrió que se le dio voz a una persona que fue miembro de eta

es un insulto y una humillación a la sociedad y en concreto a las víctimas del terrorismo su sola presencia el hecho de llamarle a una persona de estas características

es un insulto a la inteligencia y una vergüenza es una vergüenza y es un motivo más para pedir la dimisión de la directora general de e i te be

con que se le dé voz a este tipo de gente esto es lo que tenía que haber hecho el lehendakari

en nuestra televisión ni en nuestra radio eso es lo que exigimos es un insulto su sola presencia pluralidad sí evidentemente libertad de expresión sí evidentemente una cosa es eso

que no se ha arrepentido de sus hechos que fue miembro de eta que fue dirigente de eta y cuyo comportamiento es una vergüenza para la sociedad y a esta persona se le llama como tertuliano a e i te be una vergüenza inaceptable exigimos que no vuelva a aparecer

por e i te be que no vuelva a aparecer ni una sola vez en e i te be se le llamó una vez y se le llamó una segunda vez una vergüenza y una razón más para pedir

señor lehendakari usted tenía que haber dicho aquí que no está de acuerdo con ese planteamiento y con esa decisión de e i te be es un tema lo suficientemente relevante

maneiro jauna el gobierno ya ha trasladado su postura y creo que claramente

en un momento anterior habiendo cumplido ya su condena y estando en pleno derecho de ejercer sus derechos básicos y libertades fundamentales no debe ser por sí mismo

gertatu izan da señor lehendakari yo le voy a seguir haciendo también a usted la pregunta porque así estaba formulada

los socialistas no cuestionamos su posición ética estamos convencidos de que usted igual que nosotros compartimos que jamás nadie debió ser asesinado secuestrado extorsionado o amenazado por ninguna razón política ni ninguna razón de estado que nadie debe justificarlo y que debe eludir su responsabilidad pero le tenemos que pedir opinión a usted

una vez más han eludido dar la cara con mucho esfuerzo y gran entendimiento también con ustedes

desde la perspectiva estratégica debe ser un instrumento para

para reparar y normalizar la convivencia para preservar la memoria y dignidad de las víctimas para el reconocimiento del daño causado y para el mayor respeto a los derecho humanos y a la democracia este texto está muy alejado del hecho

que si es conocido por algo es por su condición de terrorista más allí de cuestionar

debe ser contertulio pensamos que recuperar todos los derechos civiles y políticos no significa en ningún caso adquirir derecho para insultar a las víctimas la dirección de e i te be

pero a un servicio público creo que debemos exigirle a quienes después de haber sido condenados por delitos de terrorismo no asumen el dolor causado y no cumplen con la ley cuatro barra dos mil ocho de reparación y reconocimiento de las víctimas del terrorismo y por eso queremos pedirle opinión

que por cierto se había confirmado días antes en la programación de e i te be antes que afrontar el asunto y rechazar a un tertuliano que ofendió a las víctimas del terrorismo

público vasco y de los principios que deben regir su funcionamiento su opinión

en la programación sino su opinión sobre la presencia en e i te be como contertulio de un condenado por terrorismo

plan estrategikoaren testua alderdi ezberdinekin adostutakoa el compromiso decidido de la dirección de e i te be con los derechos humanos y la convivencia pacífica está recogido en el plan estratégico de e i te be y como usted bien sabe dicho plan es la base principal de las actuaciones den ente

no podemos realizar tal afirmación con el mismo nivel de rotundidad para todas y cada una de las personas que toman parte en los diversos programas y debates de e i te be

compartiéramos tan loable compromiso con el mismo nivel de implicación y adhesión sin duda alguna ese sería uno de los mayores logros y éxitos que este gobierno pudiera alcanzar

errespetatzeko así quiero subrayar nuestro firme compromiso y el de la dirección de e i te be con el rechazo activo de toda expresión de violencia

y con la solidaridad y acompañamiento que se debe a todas aquellas personas que la han padecido eskerrik asko uriarte andrea unzalu jauna zurea da hitza

a la señora consejera vamos a ver usted me ha contestado con lo que le he dicho yo

que es su opinión sobre la presencia de un terrorista que hace

y la repercusión que esto tiene para las víctimas usted no me ha contestado a eso para nada usted ha tirado balones fuera usted ha hecho lo mismo

que tampoco viene a responder aquí usted ha hecho exactamente lo mismo tirar balones fuera no asumir el error con dignidad tenían que haber dicho fue un error que esta persona estuviese en ese programa fue un error que se permitiese que se insultara a las víctimas del terrorismo
en ese programa y ustedes no lo han dicho vuelven a esconder la cabeza eskerrik asko unzalu jauna

unzalu jauna creo que en la intervención anterior

el gobierno dejó bien clara su posición y su opinión eta lehen esan dudan bezala baita pertsona bat kondenatua izateak

gracias señora presidenta era la impaciencia de a ver si a la tercera va la vencida y se nos responde

sigue causando sufrimiento en esta tierra a las que fueron víctimas del mismo y desde los poderes públicos tenemos la obligación de tratar de realizar políticas de deslegitimación política y social de las acciones del terrorismo y la televisión pública vasca como ente dependiendo del gobierno vasco debe colaborar con dicho objetivo y usted señor lehendakari como máxima autoridad de ese gobierno vasco debe hacerlo

sino desde los hechos desde la perspectiva y con arreglo al cumplimiento de la ley e i te be tiene su propio plan estratégico en el que es verdad

hay que decir además que este principio no fue incluido de motu propio por la propia dirección de e i te be sino que tuvimos que ser los grupos los que introdujesemos ese punto pero muy bien una vez que está la deslegitimación dentro

no entendemos que una persona como mikel zubimendi participe en un debate de etb nos hemos enterado que este debate se va a retirar pero la solución no pasa por retirar el programa sino por elegir mucho mejor a los contertulios por seleccionar a los contertulios de acuerdo con su trayectoria personal y este grupo

que una persona de la trayectoria personal de mikel zubimendi pueda ser contertulio en la televisión pública vasca cuando lo preguntamos la directora nos dijo que lo tenía que mirar señor lehendakari

usted también tiene que hacer una reflexión profunda también lo tiene que mirar eskerrik asko llanos andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

que habiendo cumplido ya su condena está en pleno derecho de ejercer sus derechos básicos y libertades fundamentales por tanto el hecho de haber sido condenado previamente no es por sí mismo motivo de exclusión

el resto de los tertulianos de diversas sensibilidades ideológicas conocían su participación en el programa y no pusieron objeción alguna al respeto

objeto de la polémica suscitada le representan únicamente a él el gobierno vasco y la dirección de e i te be no comparten dichas opiniones

y tal y como se ha subrayado en mis anteriores intervenciones horregatik

gracias de nuevo aparte de la trayectoria criminal del señor zubimendi tiene declaraciones

o sobre el secuestro del señor aldaya que ya

de televisión pero es que además en ese programa de televisión lo que hizo fue legitimar el terrorismo porque habló de santi potros de una persona por treinta y tres asesinatos como un gran tipo y al que él apreciaba mucho usted cree que eso es deslegitimar el terrorismo alguien que siente por una persona responsable de tanto sufrimiento aprecio qué le parecería que por mucho que hubieran cumplido sus condenas un violador fuese a la televisión y dijese que otro violador

o un maltratador de mujeres le parecería normal en absoluto eso no lo tendrían que mirar sin embargo esto lo tienen que mirar es de una gravedad absoluta como es de una gravedad achacar la responsabilidad a los contertulios o sea son los contertulios los que tienen que decir

la responsabilidad reside en ustedes en que acepten como válidas y como necesarias las opiniones

es la responsabilidad porque la participación del señor zubimendi por llamarle de alguna forma en este programa solo puede responder a una

incluso a veces comprensiva con el terrorismo de eta porque esto no responde a una equivocación porque ni tan siquiera están reconociendo que se equivocaron

meditada y se han retirado el programa ha sido por presión por presión de los medios

y etb no puede convertirse en un altavoz para que terroristas condenados

realicen afirmaciones que únicamente lo que pretenden es seguir legitimando el terrorismo la violencia no tiene justificación no la tiene y testimonios como el señor zubimendi lo que pretenden es que tenga justificación y lo que necesitamos

que no den cobertura a las justificaciones de los violentos y para lograr ese fin lo que necesitamos también es dirigentes políticos convencidos de ello y créanme

en ocasiones como estas en la que usted ni ha contestado no dan ese convencimiento eskerrik asko llanos andrea amaitzeko uriarte andrea zurea da hitza

señora llanos creo y considero que he sido suficientemente clara y concisa en mis explicaciones

en consecuencia no comparte en ningún caso opiniones que reflejan una escasa sensibilidad